bueno hoy por fin vamos a hablar en condiciones de fiscalidad en este parlamento y digo en condiciones porque pese a que desde el inicio de la legislatura han sido recurrentes los debates en torno a fiscalidad en esta cámara no ha habido una posibilidad real de plantear un y profundo como saben todos ustedes como saben todas ustedes los partidos que sustentan a los gobiernos de las diferentes diputaciones forales ya han registrado o están a punto de registrar su reforma fiscal en las tres juntas generales dando así la envoltura necesaria

a la famosa foto del pacto entre el partido más alejado de la voluntad de la ciudadanía vasca

miren es curioso que quienes a veces dicen que este no es el lugar para hablar de fiscalidad entreguen mediante acuerdo presupuestario de por medio

de euskadi al partido popular y pacten justo lo contrario a lo que venía reclamando el propio consejero de economía del gobierno vasco durante todo este año pero lo que yo realmente me he preguntado en no pocas ocasiones es cómo es posible que la política fiscal de un país la dicte el partido con menos apoyo entre la ciudadanía cómo es posible que con una mayoría progresista en este parlamento y en el sentir de la ciudadanía vasca tal y como los resultados electorales

evidencian no es posible ponernos de acuerdo en llevar a cabo una política fiscal realmente justa en beneficio de toda la ciudadanía y de toda la economía vasca

este pleno monográfico porque consideramos que es uno de los debates más importantes para todos aquellos que defendemos la igualdad la solidaridad y la justicia social porque este es uno de los debates más importantes para aquellas personas que queremos bajo estos principios construir

en el anterior pleno monográfico sobre fiscalidad de febrero de dos mil trece se aprobó por mayoría de la cámara crear un foro para traer a este parlamento el debate sobre fiscalidad

de forma que esta cámara que tiene las competencias de armonización

este es un acuerdo incumplido una vez más incumplido por los partidos que ya han presentado su acuerdo fiscal regresivo un acuerdo incumplido por interés por el interés

quería sacar a toda costa unos presupuestos adelante fuese al precio que fuese que había que llevarse la justicia social por delante pues nos la llevamos por delante

pues acordamos la mayor bajada de la historia que hay que hacer oídos sordos a los acuerdos de este parlamento qué más da verdad pero aún estamos a tiempo a corregir y de cumplir con ese acuerdo de este mismo parlamento

y tratando de profundizar la posibilidad de establecer unas líneas básicas de reforma de una reforma que sea fiel reflejo del sentir mayoritario de esta cámara

y lo hemos repetido en muchas ocasiones pero lo reiteramos no existe la posibilidad de una sociedad justa sin una política fiscal justa y por eso ante esos ajustes fiscales del pnv del pp y del pse que no avanzan

absolutamente necesario traer a esta cámara un debate monográfico en el que abordar la fiscalidad en su conjunto zerga politika bati buruz hitz egiterakoan

azken hamarkada honetan preguntaba en euskera

básicamente porque la norma habitual en la última década han sido

la causa de este desequilibrio presupuestario hay que buscarla en el periodo precrisis por qué

nuestras juntas generales aprobaron sucesivas reformas fiscales con un objetivo muy claro

y de los beneficios empresariales esas reformas que se vendían como modernidad o que se vendían como mayor competitividad de nuestro tejido productivo se ha demostrado que eran falsas tan falsas como los argumentos que se emplean ahora para justificar esta bajada de impuestos porque son exactamente las mismas sean claros señores del partido nacionalista vasco señores del partido popular el objetivo es hacer que quien más tiene pague menos el credo ultraneoliberal que inspira sus propuestas está ahí

su receta da como resultado mayor desigualdad social sean sinceros y díganlo claramente

es si los socialistas vascos asumen ese credo y esas recetas yo quiero creer que no

quedan los arrestos suficientes para decir que no al programa electoral del partido popular no se equivoquen porque esta es una mano tendida un mano tendida porque de verdad euskadi puede y quiere una nueva reforma fiscal

una reforma que para salir adelante necesita su apoyo el de los socialistas de corazón por eso sumemos sumemos los votos de la izquierda de las fuerzas progresistas de todos esos valores de todos esos vascos y vascas que votaron programas de cambio social que votaron justicia social que votaron menos desigualdad

que los que más tienen paguen más y es que fíjense si es importante lo que tenemos entre manos que fueron esas reformas fiscales precrisis a las que aludía antes las que socavaron la capacidad de las instituciones públicas para financiar el gasto social y los servicios públicos

como la que ahora propone el partido popular que no es casualidad

y a las tasas insostenibles de endeudamiento en dos mil siete se rebajó el impuesto de sociedades del treinta y tres al treinta por ciento

se rebajó del treinta al veintiocho por ciento ahora en dos mil dieciocho quieren dejarlo en el veintiséis por ciento para que acabe en el dos mil veinte en el veinticuatro por ciento

dónde cuál es el objetivo que desaparezca que sea irrelevante que las grandes empresas con beneficios no tengan que pagar impuestos pues van por el buen camino

ustedes quieren limitarse a recaudar lo mínimo bajando además los impuestos a quienes más tienen cómo se van a revertir los recortes sociales de la crisis recaudando lo mínimo o es que

impide revertir esos recortes se cumple así la máxima de las políticas neoliberales si la economía va bien hay que bajar los impuestos porque la economía va bien

hay que bajarlos para que mejore ahora dice el gobierno que la economía va bien y que ya hemos pasado la crisis eso sí

le encanta al gobierno hablar de datos macro cuando bajamos al sufrimiento de tantas y tantas familias la cosa cambia porque no se olviden miles de familias siguen sufriendo la pobreza

la precariedad laboral el paro o sus recortes en la renta de garantía de ingresos sin embargo ustedes señores y señoras del pnv pactan junto al partido popular otra rebaja fiscal a las personas que más dinero tienen por qué

sencillamente porque su modelo fiscal es el mismo repito exactamente el mismo que el del partido popular que los que más tienen paguen menos y que los que tenemos menos paguemos a escote eso que no pagan los que más tienen porque no digo nada nuevo si afirmo hoy aquí que nuestro sistema fiscal no es justo verdad porque esta es una afirmación que ha sido compartida tanto por elkarrekin podemos como por euskal herria bildu como por el partido socialista de euskadi en múltiples ocasiones

sostengatzen den heinean a que sí señora castelo a que ustedes también creen en el pse que la actual sistema fiscal es injusto ustedes como nosotras como euskal herria bildu

creemos que es injusto que la recaudación esté sustentada fundamentalmente por las nóminas y por los impuestos indirectos

que las rentas de capital no paguen lo mismo que las rentas del trabajo pues si es así votemos juntos las resoluciones de este pleno para acabar con esa injusticia

y es que tenemos un sistema fiscal en el que la presión fiscal es siete coma tres puntos inferior a la media de la unión europea y esto quiere decir que anualmente en las haciendas vascas se dejan de recaudar más de tres mil doscientos millónes de euros

en el que trabajadores y trabajadoras pagan mucho más hasta un cuarenta por ciento más de media que los y las profesionales liberales y eso no es justo tenemos un sistema fiscal que permite a los que viven de las rentas y no del trabajo buscar mil atajos para pagar

y eso no es justo y es que tenemos un sistema fiscal

pagan mucho menos que las rentas del trabajo y eso tampoco es justo la injusticia es que nuestro sistema tributario no está tratando de forma similar

hoy en euskadi se trata de un modo muy diferente a los contribuyentes en función del origen de su renta o beneficio

un gran rentista con pisos en alquiler el máximo que pagaría sería un veinticinco por ciento y esta es una situación que lleva mucho tiempo enquistada

ponerle fin cómo vamos a construir una sociedad prospera con unos servicios públicos de calidad si existen impresentables que defraudan a las haciendas más de dos mil trescientos millónes de euros cada año eso es injusto

no puede tolerar que las instituciones no hagan su trabajo en la lucha contra quienes nos roban a todas las personas y por eso es necesario que las fuerzas progresistas no permitamos que esto siga así para la ciudadanía vasca es imposible entender

y elkarrekin podemos no lleguemos a un acuerdo para acabar con el fraude fiscal cuando somos mayoría

y mayoría en esta cámara por favor por la gente por la gente que honestamente paga sus impuestos

sumemos nuestros votos sumemos nuestros votos señora castelo contra el fraude fiscal no sumen los suyos a los del partido popular no lo sumen a partidos que chapotean en la corrupción

a la mitad de la población a las mujeres y eso también es injusto muy muy injusto porque como saben la política fiscal como cualquier otra política económica no es neutra desde el punto de vista de género las políticas fiscales

y hay que analizar los diferentes impactos que en función del género tiene las cargas y los beneficios fiscales una euskadi que quiera avanzar hacia una igualdad real y efectiva

en esta cuestión en elkarrekin podemos entendemos que la fiscalidad es la herramienta necesaria para

la fiscalidad es uno de los elementos claves para la cohesión social

y por eso entendemos la fiscalidad como la base para que en una sociedad las cargas se repartan en función de las posibilidades de cada persona

según las necesidades de cada una porque no debemos olvidar que solo bajo el paraguas de la justicia social seremos capaces de garantizar unos servicios públicos

de una igualdad de oportunidades real en nuestro país y para ello es imprescindible dotarnos de un sistema tributario que persiga los fines de suficiencia de ingresos de equidad de eficiencia de redistribución de la riqueza que incentive la actividad económica y la creación de empleo de calidad y que fomente la igualdad entre mujeres y hombres en definitiva una política fiscal

las fuerzas progresistas que repito somos mayoría en este parlamento

revisando los programas electorales de las fuerzas progresistas del partido socialista de euskadi

y las intervenciones anteriores que se han hecho en este mismo parlamento

y la del partido nacionalista vasco no no es que sea una pena que estas fuerzas no lleguemos a acuerdos es que sería imperdonable porque lo que está en juego es mejorar la vida de toda la ciudadanía e insistiré una y mil veces

y que es imperdonable faltar a la palabra dada en los programas electorales porque hoy es posible un acuerdo en materia fiscal muy distinto

hoy es posible si el partido socialista de euskadi quiere y desde luego en elkarrekin podemos

queremos que suelten amarras con sus pactos con la derecha y se sienten a hablar con las fuerzas de izquierda y progresistas de este país por eso hoy me gustaría hacer un llamamiento a la coherencia

y a trabajar por el progreso del conjunto de la sociedad en ese sentido e intentando aunar sensibilidades y con el objetivo de revertir las injusticias del sistema fiscal

citadas presentamos el viernes pasado el documento seis claves para una política fiscal justa compartida por las fuerzas progresistas documento que es la columna vertebral de las resoluciones que presentaremos una vez el debate sea suspendido

de seis claves que citare muy brevemente a continuación la primera promover la progresiva convergencia de la presión fiscal de la comunidad autónoma de euskadi con la media de la unión europea

y del ahorro con las del trabajo la tercera recuperemos la figura de un impuesto que sea cual sea su nombre grave de verdad a los patrimonios

luchar contra el fraude fiscal más allá de titulares de periódicos luchemos de verdad pongamos medidas concretas encima de la mesa medidas eficaces para acabar con esta lacra quinto introduzcamos la perspectiva de género en las políticas fiscales que se apliquen en la comunidad autónoma de euskadi

sentemos las bases de una fiscalidad verde en euskadi son seis puntos seis claves seis orientaciones

que deberíamos compartir como mínimo las fuerzas progresistas es decir elkarrekin podemos euskal herria bildu y partido socialista de euskadi más aun son contenidos presentes en

son el compromiso que ya hemos adquirido con la sociedad vasca son nuestra palabra podrá alguien defender votar contra su programa electoral

de izquierdas o socialista votar en contra de su programa

ojala ojala que esto no ocurra porque la ciudadanía vasca las personas jóvenes las pensionistas las desempleadas

quieren soluciones y por ello desde elkarrekin podemos proponemos a las fuerzas progresistas que seamos capaces de cumplir

en esta cámara es decir que seamos capaces de que nos pongamos al servicio de la sociedad vasca en su conjunto sin dejar a nadie fuera y que lo hagamos cumpliendo la palabra ya comprometida con euskadi eskerrik asko

un acto en madrid con el mundo empresarial para vender según sus propias palabras la diputación

el nuevo escenario fiscal curioso realmente un escenario donde que todavía que yo sepa no está aprobado pero en fin ahí va el diputado qué les va a vender el diputado general de bizkaia qué les va a decir que van a pagar más impuestos

con unas previsiones de recaudación que él mismo calificó de simple simulación qué les va a vender que aunque se baje el tipo del impuesto de sociedades se han encargado ustedes

pues no señorías no se lo creen ni ustedes mismos bi mila hamazazpiko diru bilketari dagokiola denetarik entzun dugu historikoa dela

pnv pse y pp han acordado recientemente una modificación fiscal que viene a seguir

vuelven a bajar el impuesto de sociedades adornándolo con modificaciones en las deducciones unas deducciones que ya en el ejercicio dos mil trece les dijimos que no iban a ser efectivas

eliminando de raíz cualquier atisbo del impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas sí un impuesto sobre la riqueza

se trata de una tasa que prima la distribución de la riqueza para que paguen más los que más tienen en definitiva vuelven ustedes a darle un tajo a la capacidad recaudatoria y lo que es a la capacidad redistributiva del sistema impositivo vasco siguen ustedes la misma senda de siempre contentar a los que más tienen

porque eso es lamentablemente lo que ustedes han hecho lo hicieron en la contrarreforma del dos mil trece

lo hicieron en el dos mil siete bajando el impuesto de sociedades y lo hicieron en un ejercicio de seguidismo ramplón al estado español borrando del mapa tributario el impuesto de patrimonio durante dos años

ustedes siguen la receta clásica del liberalismo que lo siga la derecha es lo normal

desdecirse de medidas fiscales realmente progresistas y en post del bienestar común

o cruzar la línea roja que ellos mismos se habían puesto

al tipo del impuesto de sociedades aun no resultando sorprendente porque no es la primera vez que lo hacen

o incluso incongruente pero en esas están ustedes comendados por el propio lehendakari su partido en esas están en contentar a la gran patronal

que les aplauden con las orejas antes en privado ahora ya en público y a la vez intentan hacer creer a la ciudadanía que es por el bien de todos

con recetas cortoplacistas con recetas que ya se han demostrado erróneas y que a los sumo

vistoso de recaudación en periodos de crecimiento

y la clase trabajadora en definitiva hacen que la desigualdad que la crisis económica se ha encargado de hacer cada vez mayor

intrínseca de nuestra sociedad por su voluntad política porque ustedes así lo quieren porque miren hay más de ciento veintiocho mil personas en paro y

al dos mil ocho todavía hay setenta mil personas menos ocupadas que antes de la crisis en euskadi y navarra hay ciento treinta y siete mil puestos de trabajo menos que en el dos mil ocho

una visión nacional de euskal herria estarían hablando de

en el salario mínimo en la pensión mínima hay mucho que aprender hay muchos ejemplos que ustedes pasan por encima sin atender a las diversas realidades de este país porque para que este año haya ocho mil seiscientos veintiséis personas menos desempleadas se han tenido que hacer más de novecientos cincuenta y ocho mil contratos

el siete coma sesenta y cinco por ciento de estos contratos han sido indefinidos

tela nueve de cada diez contratos evidentemente son temporales y de estos más de la mitad duran menos de treinta días menos de treinta días y lo peor de todo el peor de las condiciones salariales ínfimas que tienen nuestros jóvenes y nuestros trabajadores y trabajadoras el mejor ejemplo de la precarización es por ejemplo la estadística de ingresos netos medios por los hogares que según la encuesta del ine ascendía en dos mil dieciséis

euros menos que en el dos mil ocho ocho años y los hogares tienen dos mil euros menos para vivir pero todo va bien agian datu makroekonomikoak

el pib de la capv del dos mil diecisiete ha sido un diez por ciento superior al pib del año dos mil siete

en una mayor recaudación ya que la recaudación final del dos mil diecisiete restando esos ingresos extraordinarios del cupo ha crecido poco más de cien millónes en diez años

de qué me están hablando no es para echar cohetes diez años en los que la situación de nuestro país

con mayores necesidades sociales y que ya hemos visto cómo los presupuestos no atienden debidamente mayores necesidades fruto de una sociedad cada vez más desigual

ante la que ustedes hacen oídos sordos escudándose en esas estadísticas que tanto les gusta comparativas con el estado español una sociedad en la que a pesar de la invisibilidad que aun recibiendo prestaciones sociales no sale de la pobreza por lo tanto algo no se está haciendo bien no vale el mantra de que ya nos gustaría hacer más pero no hay para más porque sí lo hay pero ustedes prefieren seguir así porque la presión fiscal de la capv es el treinta y dos por ciento y en la unión europea del veintiocho

es de un cuarenta y uno coma cinco por ciento por lo tanto hay margen hay margen si queremos una sociedad más avanzada

hay margen para que el capital y los beneficios empresariales hagan realmente la aportación que deben a la sociedad porque además

las políticas públicas salen beneficiadas de las políticas públicas y con este contexto señorías es irresponsable por no decir que es directamente mentir a la sociedad trasladar a la opinión pública que pagamos demasiados impuestos eta horregatik

gizarte ongizate eredu bat eraikitzeko nuestra propuesta fiscal va en la línea de quesean quienes más tienen los que soporten el incremento de la presión fiscal en un doble sentido aumentar la recaudación y avanzar

una propuesta que tiene varios ejes que se concretan en diferentes propuestas que hoy

medidas para corregir la descompensación que ya hemos comentado en la carga fiscal sobre las rentas del trabajo que es muy superior

aumentando la tributación por lo tanto sobre las rentas de capital y rendimientos de actividades empresariales y profesionales medidas

porque para construir un sistema impositivo que responda a las necesidades del país y de sus gentes necesitamos soberanía fiscal plena necesitamos todas las herramientas posibles en beneficio de la sociedad vasca y medidas para el reforzamiento en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal

que proteja nuestro medio ambiente de las agresiones exteriores y que luche de una manera efectiva por el cambio climático ardatzak hauek izanik hainbat neurri proposatzen ditugu

hemen kudeatzeko soberanía fiscal he dicho sí porque creemos que es fundamental para el bienestar de nuestra sociedad

de país que recoja la fiscalidad y sus medidas como una verdadera prioridad en la construcción nacional porque para todo ello también

porque aquí también queda camino por recorrer y lo podemos recorrer juntos y juntas porque ya basta

estabilidad que no es más que parálisis autocomplacencia e inercia sus pactos

señorías del pnv del pse con el pp como en el techo del gasto

traen que ahora les veamos protestar por el destino final

ahí tenemos por ejemplo las declaraciones del diputado general de álava pidiendo más capacidad de decisión sobre nuestros recursos en concreto sobre superávit recaudatorio pero estas quejas no valen son ustedes los que propiciaron esta situación

como han elegido profundizar en una contrarreforma fiscal errónea que como ya he dicho antes no han cerrado porque llegará una vuelta de tuerca más como pide el partido popular envuelta una vez más en el beneficio para los que menos tienen

el debilitamiento de la capacidad del sector público el debilitamiento de las políticas sociales públicas pero una vez más será su elección política
estamos a tiempo de evitarlo eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señor bollain para no ser el lugar donde corresponde hablar de este tema

al año desde hace cinco años proposiciones no de norma mociones interpelaciones de todo ahora sí le voy a decir una cosa probablemente esta sea la cámara que más debate sobre fiscalidad

y que nosotros lo que hemos dicho siempre es que si tanto interés tienen en el debate fiscal donde deberían plantearlo es donde se pueden aprobar es en las juntas generales

no he visto que ninguno de los dos grupos proponentes de este pleno de hoy lo hayan planteado en ninguna de las juntas generales

lo plantean aquí porque al final pues bueno pues lo que salga de aquí serán recomendaciones

no van a tener efectividad y segundo es falso ha quedado claro que no es un pleno para hablar de fiscalidad han pedido este pleno para criticar el acuerdo fiscal al que llegamos

pero sin embargo ese trámite lo tienen hoy también en las juntas generales están tramitando las normas forales que regulan el impuesto sobre sociedades

que benefician a los ciudadanos y ahí es donde pueden hacer

que no les gusta porque yo le tengo que decir a los dos que son cuanto menos contradictorios son contradictorios porque nos están venga hablar de europa de la presión fiscal en europa y cuando

igualamos el impuesto sobre sociedades lo más parecido a lo que hay en europa en la media de europa ustedes hombre seguimos teniendo los tipos más altos de europa y hasta dentro de dos años no vamos a estar abajo o sea nos estamos equiparando a europa en el impuesto sobre sociedades

esto de la presión fiscal inferior a la media de europa hombre también podían hacérselo

porque dónde está el diferencial en esa presión fiscal inferior a la europea dónde está

dónde estará en los impuestos que gravan el consumo sí sí sí quieren que les diga cuál es el diferencial que tenemos por ejemplo en el dos mil catorce

el tipo impositivo implícito del consumo aquí era del quince coma dos por ciento en alemania del diecinueve coma nueve por ciento que es la media europea y en dinamarca

cuando aquí alguien está planteando hay que equiparar la presión fiscal lo que está diciendo es que hay que elevar la imposición que grava el consumo todo tipo de consumo

entonces díganlo claramente y eso es todo el mundo los ricos y los no tan ricos todo el mundo

sabe otro diferencial dónde está entre nosotros y europa en esa presión fiscal pues en eso que se llama

aquí cero en alemania cero en dinamarca el trece por ciento y en las pensiones se lo ha mirado

alemania catorce coma nueve dinamarca veintitrés coma siete

rentas les subamos la imposición porque ahí está el diferencial por lo tanto

cada vez que alguien viene aquí a decirnos que hay que igualar que hay que subir la presión fiscal sabemos perfectamente que se refiere a que nos quieren subir a todos la presión fiscal

sí sí especialmente a los que menos ganan sí porque al final todo consiste en que hay que subir el iva y los impuestos especiales

sobre fiscalidad y no me voy a molestar mucho en defender el pacto al que llegamos

que lo están haciendo muy bien entre otras cosas porque todo el mundo sabe lo que hemos hecho que es mejorar sustancialmente la competitividad de las empresas para que se cree más empleo ahora bien nos dice el señor bollain que si la economía va bien bajamos los impuestos y cuando va mal bajamos los impuestos oiga yo le tengo o sea por favor no nos

si usted no es consciente que en el año dos mil trece aquí se han subido todos los impuestos en plena crisis económica los que gravan el consumo el irpf todos se subieron

unos a través del congreso de los diputados y otros a través de las juntas generales todos los impuestos o no se acuerda usted cómo a mariano rajoy todo el mundo le ponía a parir porque subía los impuestos cuando nuestro programa era bajarlos

pues hay que ir tapándolo ahora en españa ya ha habido una

y se anuncia otra aquí seguimos con la subida de impuestos del dos mil trece y cuando hablamos de subida de impuestos del dos mil trece yo le voy a dar unos datos

hombre hay que hablar de recaudación y de número de contribuyentes ustedes se quejaban de que en impuesto de sociedades se ha recaudado menos claro ustedes a lo mejor no han contado que hemos perdido treinta y cinco mil empresas en nueve años

no sé si son conscientes claro y se recauda menos oiga es que tenemos

menos que hace nueve años que en el dos mil ocho y

oiga ocupados en el país vasco en el año dos mil ocho

a finales del dos mil diecisiete hace dos meses

personas menos cotizando ocupados

se ha incrementado por qué se ha incrementado porque bajamos los impuestos o porque los subimos porque se subieron

sabe usted cuánto pagaba cada ocupado de irpf en bi mila zortzi le voy a decir cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho euros sabe cuánto paga hoy cada ocupando

porque es muy fácil hacer la división recaudación de irpf entre número de ocupados y le salen esos datos es decir cada ocupado

que en el dos mil ocho y

la renta familiar no se ha incrementado en estos años no se ha incrementado pero los impuestos sí los impuestos sí la renta familiar no y no se ha incrementado por dos motivos uno porque los sueldos no han subido y dos porque los impuestos sí que han subido

y ahora que ya estamos en niveles de recaudación superiores a los que teníamos en aquella época

que corresponde devolverles a los ciudadanos ese esfuerzo que se les ha pedido sí claro que sí claro que sí claro que sí

ustedes son fantásticos hay que subir el sueldo a la gente sí para que usted recaude más

y las familias dispongan de más dinero devuélvaseles a las familias lo que se les ha pedido que aporten en estos años de crisis es algo tan simple

son ustedes del siglo diecinueve o así en toda europa solo hay un país que lo tiene y es francia el único que lo tiene macron ha anunciado que lo quita en el dos mil diecinueve y yo no sé sí usted se acuerda

porque le pusieron ese impuesto ese impuesto es la mitad del que se paga aquí

de lo que se paga aquí y qué le paso a francia pues que

sabe usted cuantos contribuyentes ha perdido gipuzkoa en el impuesto de patrimonio en los últimos dos años setecientos setecientos ha perdido setecientos de los grandes o de los pequeños

y en otros impuestos en gipuzkoa

que paguen los ricos oiga esos ricos ya no pagan en gipuzkoa se les han ido

casi setecientos es que son cifras de la diputación de gipuzkoa

dónde están le voy a decir quien ha aumentado la recaudación de los tributos en gipuzkoa los ciudadanos los trabajadores las trabajadoras los profesionales los autónomos y las empresas

ya no están y usted les puede grabar el ochenta por ciento

va a seguir siendo cero ahora quedará usted muy bien dirá

cero si esto ya nos lo conocimos aquí nosotros desde hace desde hace

pagamos más impuestos o pagamos demasiados impuestos pues claro que pagamos demasiados impuestos yo no conozco a nadie que diga que paga pocos impuestos bueno sí ustedes

si el dinero si le sobra pues claro que pagamos nosotros

no conozco a nadie en la calle qué diga que pocos impuestos pago y cuando hacen ustedes comparativas con países europeos

que tiene unos tipos muy altos muy altos en todos los impuestos pero luego resulta que tiene un escudo fiscal que engloba todos los impuestos incluidos los municipales que

incluidos los impuestos municipales que no pueden superar el cincuenta y dos por ciento hacemos eso aquí copiamos a dinamarca

nosotros sí estamos planteando y sí queremos el debate fiscal nosotros queremos

se ha recuperado la recaudación la hemos superado incluido descontando seiscientos millónes del acuerdo del cupo de los años anteriores incluido eso

descontando seiscientos millónes de esta mayor recaudación del acuerdo del cupo y toca devolver a la gente el esfuerzo fiscal que se le ha pedido estos años

de las familias lo que no se puede pretender es que hay que subir el sueldo de las familias nosotros no nosotros subimos la recaudación pues no nosotros estamos

señora pinedo vamos a ver

no no nosotros hubiéramos ido mucho más allá claro

es un pacto porque nuestra propuesta pasa por evidentemente bajar la factura fiscal de los ciudadanos y de las familias

sí sí cada ciudadano vasco se recauda más más de

por cada ciudadano vasco comparado con los ciudadanos españoles

estamos pagando mil quinientos euros más que el resto de los españoles

que también la suma es muy fácil sabe coge recaudación total del irpf y lo divide entre el número de habitantes por ejemplo

y eso son las cifras que salen estamos pagando el irpf más alto de españa y si ya si nos comparamos con madrid

mire los más modernos como los europeos no tienen sucesiones de padres a hijos

y el irpf es el más bajo por qué se cree usted que se han trasladado a madrid

aquí creo que vino una fueron a otros sitios

pero es que además de mirar la fiscalidad de las empresas de las sociedades los directivos estos tienen la mala costumbre de mirar ellos cómo quedan y cuánto les va a salir a pagar si van a madrid a valencia o a bilbao y es que aquí le salía a pagar mucho más por lo tanto ganaban menos

cuando se va a trasladar de un sitio a otros y cuando puede elegir pues claro

y ahora en la reforma que se está tramitando hay una propuesta para que directivos y tal hacer una cosa rara a ver si los directivos estos importantes pues empiezan a pagar aquí y cotizar aquí y por qué

las diputaciones han planteado eso a lo mejor será porque han detectado que los directivos que ganan mucho dinero

usted quiere recaudar más o menos si quiere recaudar más lo interesante es tener

ahora si los echan recaudará cero y entonces como siempre nos toca pagar a todos a los demás a los que estamos aquí por lo tanto le repito lo que toca ahora es

el dinero el esfuerzo que se le ha pedido durante estos años de crisis

ha disminuido mientras la recaudación aumentaba

las ayudas a las familias las ayudas a la conciliación a los hijos a las hijas a la dependencia tienen que tener evidentemente en la reforma fiscal que hay que hacer en el irpf una importancia

porque eso sí es hacer justicia hacer justicia no es

y luego por aquí te voy a dar una subvención no oiga no hace falta no hace falta dejémosle a la gente con el dinero

y por lo tanto hay que aumentar las deducciones de carácter personal y el ahorro oiga pero si tenemos las rentas del ahorro si tenemos de los tipos más altos de europa

y más altas que en españa pero de qué hablan sí sí las más altas las más altas

tenemos de los tipos más altos de toda europa que gravan las rentas del ahorro usted le llama de capital yo le voy a llamar rentas del ahorro

claro que las grava dos veces primero cuando se obtuvo el rendimiento

como el patrimonio que es evidentemente una figura obsoleta

y llevamos cuarenta mareando la perdiz subiendo y bajando por cierto que alguien de izquierdas dijo que suprimirlo era muy de izquierdas

se aplican el cuento y evidentemente hay que mejorar la lucha contra el fraude fiscal pero en eso oiga estamos todos hace mucho tiempo y somos pioneros en adoptar medidas no solo contra la lucha contra el fraude fiscal sino contra la elusión fiscal

que es un término distinto pero las tenemos aprobadas hace un año toda esa normativa y supuestamente estábamos todos de acuerdo no dejémosles trabajar a las diputaciones forales

en gran parte el diferencial de recaudación que tenemos los vascos con el resto de españa probablemente es porque nuestras inspecciones como tenemos tres para dos millónes de personas

digamos que está bastante más contralado que una sola para toda españa pero bueno en cualquier caso lo que es evidente palpable y demostrable es que los impuestos se han subido que las rentas

y que por lo tanto hay que devolver a las familias el esfuerzo que se les ha pedido eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

los socialistas vascos como siempre creemos pertinente cualquier debate sobre la suficiencia de ingresos para garantizar los servicios públicos y el progreso

como siempre creemos que este parlamento en el que decidimos todos los días sobre esos servicios públicos y sobre el apoyo al progreso económico es el espacio adecuado

es más los socialistas vascos acabamos de ratificar que queremos que el próximo estatuto incorpore expresamente la capacidad de que aquí decidamos ese sistema

literalmente lo que queremos que se tenga en cuenta en nuestro autogobierno

el sistema tributario no solo surte a las instituciones de los recursos necesarios para financiar las políticas públicas sino que es garantía del tratamiento igualitario

esencial para la redistribución y la solidaridad de ahí que las decisiones que se adopten sobre la fiscalidad deben de tener la máxima transparencia y control democráticos por ello lo conveniente es atribuir al parlamento vasco la potestad para regular normativamente

atribuye a los territorios históricos yo espero los socialistas esperamos que los dos grupos proponentes de este pleno ambos y sin ningún tipo de matiz

sin tener que pedir nada a nadie porque no sería muy explicable forzar este monográfico en este parlamento para luego negarle la potestad a este mismo parlamento para determinar esos ingresos salvo que ustedes vengan en este momento a otra cosa y me van a permitir que piense que vienen a otra cosa

y repasada la hemeroteca del último año porque no me ha hecho falta ir tampoco

ustedes no han venido aquí a definir el programa marco sobre ingresos en esta legislatura ustedes han venido y lo saben a excusar su propia incapacidad

acordar por dos veces consecutivas cómo distribuíamos los recursos públicos en los presupuestos de esta comunidad autónoma por dos veces en sendos debates en un mismo año acordándose de los ingresos solo

su posición para no llegar a acuerdos esa mano tendida que siempre saca

por dos veces trajeron iniciativas aparentes mediáticas al fin y al cabo que es lo que buscan para intentar justificar diferencias en lugar de mojarse

por dos veces les dijimos que estábamos dispuestos a pactar con ambos y por dos veces

popular y el partido popular ha sabido aprovechar ese espacio que ustedes no han querido ocupar

hoy se olvidan de decirlo se olvidan intencionadamente también que hace ahora un año rechazaron uniendo sus votos a los del partido popular esos a los que usted dice que es impuro por corruptos

para evitar la celebración de un pleno monográfico como este que hoy han reclamado

y abro comillas porque según ustedes no consideraban que un pleno monográfico fuera el lugar adecuado para realizar un debate serio y de calado sobre nuestro sistema fiscal curioso verdad porque la primera frase que ha utilizado el señor bollain hoy en la presentación de este monográfico ha sido

serio y de calado sobre nuestro sistema fiscal en fin esa es la evolución mi hija diría que son los pokemon y yo me pregunto

en esa posición en ese pensamiento o es que simplemente no han cambiado piensan ustedes lo mismo o su propuesta tiene un interés más inconfesable y espúreo la verdad es que yo después de los debates de este último año de los cuatro últimos debates más allá de interpelaciones y preguntas

por si todas estas certezas fueran poco ustedes han presentado públicamente el pleno monográfico

a los grupos progresistas y en concreto al partido socialista

llega muy tarde tanto como cuatro años tarde

o es que ignoran intencionadamente con esa reforma se profundizó en la progresividad que se incrementó la tributación de las rentas superiores a los noventa mil euros que se aumentó la tributación de las rentas de capital

no lo ignoran verdad pero lo obvian interesadamente

aquí en esta tribuna porque esta tan denostada reforma fiscal en la que ustedes se han entretenido

si uno las dos más de un noventa y cinco por ciento es la que luego ustedes aprueban allí donde gobiernan y me imagino que saben a qué me estoy refiriendo me refiero a la reforma fiscal de navarra

entre lo que dicen desde la oposición y lo que hacen allí donde gobiernan en materia fiscal

a pedir una convergencia fiscal con europa pero ocultan que hablando de tipos nominales

a pasear en esa europa convergente a la que ustedes se encomiendan el tipo nominal de sociedades es del veintidós por ciento a ello se encomiendan

que aquí se deje ese tipo nominal en un veinticuatro por ciento aclárense yo no sé lo que me están pidiendo nuestra referencia tiene que ser ese veintidós por ciento europeo vienen a pedir una aproximación de rentas de capital y de trabajo

que ya se hizo una aproximación en el dos mil trece y que esa dualidad que todos compartimos debe tender a desaparecer la mantienen ustedes también

paga menos que un contribuyente vasco en la misma situación curioso eso lo han aprobado ustedes allí elkarrekin podemos

que se cuente lo que se hace cuando se gobierna ahora estamos aquí joe no me hables de lo que hago en navarra no claro que le hablo de lo que hace en navarra y es que hay que tener coherencia y usted me la reclama y yo se la reclamo

endurecer las condiciones por ejemplo de aquellos pensionistas que complementan su jubilación con el ingreso del alquiler por ejemplo de una lonja de ciento cincuenta euros mensuales que no se les olvide que además puede ser el fruto del ahorro de su vida porque eso es lo que ustedes están proponiendo porque saben que los grandes rentistas me imagino que lo saben sé que lo saben supongo que se refieren a los fondos de inversión no asimilados no tributan por el irpf

en materia fiscal vienen también a proponer la lucha contra el fraude fiscal como si fuera un tema nuevo ya se lo han dicho llegan tarde y le repito como hemos hecho a lo largo de los debates que se han producido durante todo este año dos mil diecisiete que uno de los puntos más importantes sobre los que se debatió

fueron precisamente sobre este tema o es que acaso están dudando ustedes del trabajo que se desarrolla en materia de fraude fiscal luego este tema en el discurso ustedes no han venido a esto verdad que no

vienen a emplazar a los socialistas y lo ha dicho pero ya que lo han propiciado

pero no se han querido oír les voy a agradecer la oportunidad de poder volvérselo a explicar por quinta vez a ustedes

de que queremos los socialistas cuando hablamos de fiscalidad intente por lo menos además de escucharme

que a nosotros nos costó forzar cuatro monográficos en dos legislaturas

de nuestros objetivos no todos una gran parte de ellos este no es el primer debate de fiscalidad de esta legislatura como cada febrero

no han sabido capear sacan a pasear el debate fiscal la primera vez que ustedes y nosotros pudimos contrastar opiniones fue en febrero del año pasado en febrero del dos mil diecisiete cuando un monográfico para ustedes no estaba a la altura de las circunstancias

porque es totalmente vigente lo que empecé diciendo en aquel debate les decía y abro comillas compartimos con los proponentes que la fiscalidad es un instrumento una herramienta necesaria para construir un proyecto de país que nos haga progresar como sociedad que nos permita contar con servicios públicos que cubra las necesidades de los ciudadanos

una de las herramientas más importantes para lograr mayor igualdad solidaridad justicia social construir una sociedad más justa

para sustentar el mantenimiento de los servicios y prestaciones públicas para redistribuir eficazmente la riqueza entre la población y para impulsar el crecimiento y la creación de empleo

suscrito con el partido nacionalista porque creemos que es necesario preservar un sistema tributario equitativo suficiente que garantice un óptimo equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos los socialistas no creemos en los debates de subir o bajar impuestos

queremos tener y cómo los queremos pagar y nuestra posición sobre el cómo es también clara que paguen todos y que paguen más quien más tiene

así empezaba yo hace un año en aquel primer debate sobre fiscalidad les hemos dicho que nuestra palabra no caduca y fíjense he podido una por una repetirle hoy

que dije aquí hace un año y no espero por ello un titular resultón

elkarrekin podemos sacó a pasear los recargos fiscales ya no se necesitaban la reforma porque había encontrado otra cosa más original y saben qué dijimos los socialistas además de repetir el concepto de fiscalidad que no me he cansado de repetirlo cada vez que esta

uno realizar una evaluación de los resultados de la reforma efectuada porque nos comprometimos a que trascurrido tres años desde la reforma del dos mil trece

y las virtudes y defectos que las modificaciones que se habían puesto en marcha tendrían y precisamente

haciendas vascas eso sí sin titulares de prensas sin urgencias

que necesita este tema y del segundo compromiso que le dije que teníamos es que a la vista de aquellos datos y de aquellas conclusiones sobre el cumplimiento o no de los objetivos

pasó el tiempo vino la primavera el verano llegó el otoño y a ustedes el debate de fiscalidad

se les ponen los presupuestos delante y entonces sí cuando se les ofrece expresamente negociar con ustedes pues ustedes volvieron al mismo juego

el banderín del oportunismo esta vez volviendo otra vez a lo de la reforma de todo el sistema

a cinco días de refrendar o no los presupuestos de la comunidad autónoma para el dos mil dieciocho y a dos días de haber solicitado este ahora sí válido y adecuado pleno monográfico y tuvimos un nuevo debate hace escasamente dos meses y saben qué les dijeron los socialistas hace dos meses desde esta pues que podíamos coincidir con ustedes en las líneas generales de su discurso el famoso tema de la convergencia con europa en continuar en la lucha contra el fraude fiscal

en la tributación de la riqueza entre otras cuestiones pero que no compartíamos por las concreciones esas que supuestamente ustedes presentaron en prensa que es como funciona hoy también lo ha dicho hemos presentado en prensa bueno a ver si algún día tiene por costumbre además de a prensa presentarlo a este parlamento y así podemos tener todos un poquito más de conocimiento

de qué es lo que nos proponen para que además para ser formaciones que ustedes presumen de participativas pues no sabemos muy bien ni con quién las acuerdan ni cómo las calculan porque de hecho a unos en aquel mes hace dos meses les salían por un lado mil seiscientos cincuenta euros y en cambio a otros si hacían las cuentas mil doscientos cincuenta en fin yo no sé hoy cuando vengan

con una sola excusa que nada tiene que ver con un debate que para nosotros los socialistas debe ser siempre de utilidad para conseguir recursos para sostener servicios públicos

y que para otros para ustedes solo sirve para vestir sus discursos y sobre todo para vestir ese miedo que tienen a comprometerse

y que la han desestimado porque no quieren mancharse ustedes no quisieron pactar por tanto no está legitimado para venir aquí a emplazar absolutamente

hay una cosa muy recomendable para hacer política salvo que para lo que estén aquí sea para otra cosa y se llama principio de realidad y se lo voy a explicar señor bollain si los ciudadanos no te confieren la suficiente confianza para lograr todo lo que dice tu programa electoral intenta sumar para influir en la dirección

doce como en el dos mil dieciséis dice con claridad que la fiscalidad es una herramienta de solidaridad que es el instrumento con el que llevamos a la práctica

el progreso y las inseguridades una sociedad en la que se reparten las cargas

y se redistribuyen los recursos según las necesidades también de cada uno en todas y en cada una de nuestras aportaciones de nuestros discursos que ya sé que los tiene como referencia como libro de mesilla de noche nos habrán escuchado decir que la fiscalidad tiene que cumplir

dotar de recursos para el mantenimiento de los servicios y prestaciones públicas es decir garantizar igualdad y solidaridad redistribuir la riqueza entre la población es decir actuar con justicia social e impulsar la modernización y el crecimiento de la economía es decir buscar el progreso colectivo

el para qué para nosotros sigue invariable y esto lo conseguimos traducir en dos mil trece en una reforma que consiguió pasar de un presupuesto de recortes de mil quinientos millónes en gasto de empleo ayudas sociales e innovación a un presupuesto

nos permitió pasar de la resignación de los recortes a la consolidación de los servicios públicos

nos permitió pasar de intentar gestionar el presente a preparar

del futuro y nos permite haber pasado de presupuestos de nueve mil quinientos millónes a presupuestos de once mil quinientos nos permite disponer a fecha de hoy mismo

para atender nuestras obligaciones aumentar gasto social y prever nuevas inversiones la reforma fiscal está hecha y funciona

que no acompañan al discurso que se ha venido manteniendo pero es igual cuando los datos no acompañan pues tiramos

sí del tema medio no el último no lo voy a tener en cuenta porque no me viene bien pues oye tiro de los últimos tres años como si no hubiera ninguna otra causa que lo que dicen los artículos de una normativa fiscal como si la normativa fiscal se aplicara sin tener en cuenta una situación de las personas de las empresas y del entorno la reforma fiscal es más justa y es más progresiva y no afectó

pero quedaba algo quedaba perfeccionar el impuesto de sociedades condicionado por los lastres de la crisis económica que también también sufrían nuestras empresas y eso es en lo que estamos ahora en corregir ese impuesto específico el que las empresas deben pagar y pagarán más señorías pagarán más porque se recaudará

más y lo estamos haciendo aunque el partido popular podemos y bildu se sientan especialmente cómodos en el debate este simplista de subidas o bajadas de puntos nominales de subidas o bajadas de quienes defienden y no me han defraudado que no hay mejor sitio para el dinero que el bolsillo de los ciudadanos olvidándose el coste que tiene atender

y de quienes defienden la confiscación del beneficio que generan quienes invierten en empleo en producción y en modernización del país

los socialistas nos vamos a negar a ese debate nos negamos y repetimos el debate fiscal que nosotros queremos es el que versa sobre la garantía de servicios públicos

una fiscalidad que acompañe el progreso económico y que atienda siempre a criterios de justicia de equidad de progresividad y de eficacia no me voy a cansar de repetirlo por eso en nuestro programa electoral señor bollain ese que se lee usted con tanta fruición no hablamos

en el acuerdo de gobernabilidad con el pnv no hablamos de tipos nominales y en nuestra ponencia política no hablamos de tipos nominales porque no ha sido ese nunca

lo que dice nuestro programa electoral y lo que dice nuestra ponencia política aprobada en el último congreso es que el debate sobre la suficiencia de ingresos para sostener servicios públicos no sé si le ha quedado claro todavía pero todavía se lo podré decir un par de veces más

para hacer pagar más a quién más tiene y eso es lo que propugnamos no propugnamos ninguna otra cosa y el compromiso con nuestros electores señor bollain ese que a ustedes tanto les preocupa en cuanto al impuesto de sociedades es el siguiente se lo voy a leer literal yo no sé dónde busca usted pero yo le busco literal nuestro programa electoral dice revisar reducir o eliminar bonificaciones del impuesto sobre sociedades que no vayan destinadas a crear empleo de calidad proteger el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética o realizar actividades

y esto es lo que estamos haciendo establecer el mínimo de la cuota efectiva en el impuesto de sociedades en el dieciocho por ciento de la base imponible

y en el preacuerdo con el partido nacionalista de octubre no habíamos conseguido moverlo del trece lo hemos dejado en el punto que por cierto nos propuso eh bildu el año pasado

así que quienes han montado este pleno con el único fin de afearnos alguna posición e intentar aparentar una alianza alternativa que no existe porque no suma les diré

ni regresión dentro del partido socialista que cumplimos con lo comprometido y que por cierto es una reforma muy muy parecida a la que ustedes han hecho junto con eh bildu izquierda unida y el propio partido nacionalista vasco en navarra

casi ninguna empresa es más según los últimos datos publicados ya que todo el mundo utiliza los datos como les parece

las empresas en la más favorable pagan un quince por ciento en navarra y que yo sepa allí ustedes no se consideran ningunos judas sino todo lo contrario si buscan ustedes titulares de prensa sacan pecho con la reforma fiscal que han hecho allí es más

el rumbo marcado es el correcto porque en palabras del experto a la pregunta es posible bajar el tipo y quitar las deducciones contestó sí oye escueto claro conciso es más eficiente económicamente sí

dice porque la eficiencia económica te exige que graves los beneficios de todas las empresas en todas las actividades es posible bajar el tipo

y que el impuesto sea más eficiente y se recaude lo mismo

señor bollain el importante no es el tipo nominal es el tipo efectivo

en ese y no en otra cosa se lo han repetido hasta la saciedad y creo que usted puede comprenderlo que tiene posibilidad de comprenderlo aunque luego usted siempre vaya a ese discurso simplista y ramplón

muchas más empresas que hasta ahora estaban exentas porque se bonificaban todo

vamos a recaudar más y hace dos días han presentado los informes técnicos económicos que me imagino que seguirán con la misma seriedad que los presentaba helena franco cuando era diputada de hacienda en gipuzkoa que no los hacían así digo yo lo que se les ocurría por la noche en casa

de eh bildu en las juntas ni por la portavoz de podemos simplemente han dicho pues me cuesta creerlo hombre nosotros tenemos paciencia y sabemos esperar los resultados se verán

pero veremos cómo la recaudación por el impuesto de sociedades mejora

yo le digo por qué estamos contentos los socialistas porque somos la única izquierda que le guste o no le guste señor bollain en este país para conseguir una fiscalidad más justa esa que usted aplica en navarra que garantiza a todos los ciudadanos la consolidación y la ampliación de sus derechos y lo hacemos porque somos la izquierda que garantizamos la recaudación para nuestros servicios públicos pero también somos la izquierda que gracias a esta influencia aportamos

las empresas si quieren que quieren invertir y que quieren crear empleos sino la estabilidad que reclama la sociedad vasca también de aquellos que votan a otras fuerzas que se llaman de izquierdas y por cierto no quiero que se me pase por alto

esa que ustedes cuestionan tanto y que para nosotros es esencial y que lo será también en nuestras propuestas de resolución hoy por la tarde y que ustedes parece que pretenden

en la lucha contra el fraude fiscal porque dimos la batalla casi en solitario los socialistas

sobre el tema del fraude fiscal fuimos los socialistas señor bollain y no me voy a cansar de decírselo quienes a través de una enmienda presupuestaria

hay que aprender a negociar se lo he dicho también en alguna ocasión quienes conseguimos que se hiciera un informe actualizado sobre el fraude fiscal

fuimos los socialistas señor bollain quienes propusimos y logramos la interconexión entre administraciones cruzar datos

en la detección del fraude y fuimos nosotros quienes conseguimos que se creara por primera vez en la historia la comisión de lucha contra el fraude fiscal sí eso que otros quieren llamar observatorio pero que ya funciona una comisión que da cuenta a este parlamento de forma periódica de las acciones que ponen en marcha de forma coordinada las tres administraciones vascas

y de los resultados que van obteniendo y que están ampliando su red de información también fuera de españa

a quienes atentan contra los servicios públicos y los derechos de todos por no pagar lo que deben la lucha contra el fraude será una cuestión primordial para los socialistas no hasta ese cincuenta por ciento que ustedes marcaban sino hasta que no allá un solo euro que se escape por el desagüé sin pagar lo que le corresponde voy a ir terminando y lo voy a hacer

qué es un debate de fiscalidad los socialistas creemos que hay que estar siempre atentos a los ingresos y los gastos y tenemos el compromiso que lo sepa señor bollain de una nueva revisión que evalué nuevamente la reforma del dos mil trece junto con los ajustes que se van a producir

evaluar y valorar la eficacia y la eficiencia y corregir

en eso hemos estado y en eso vamos a seguir estando

aunque a ustedes no les guste que siente la ciudadanía en forma de servicios públicos y las empresas en forma

y eso les guste o no nos permite adoptar políticas que además pueden corregir las desigualdades sociales las desigualdades económicas y las desigualdades laborales porque para eso y no para otras cuestiones es para lo que sirve la fiscalidad pero ya les decía ustedes no han venido a debatir de esto han venido a seguir exponiendo sus frustraciones por las dos ocasiones

luego me dice usted que me tiende la mano para un acuerdo pero sí ya lleva usted dos oportunidades de darme la mano durante el dos mil diecisiete vamos a ver si se corrige usted en el dieciocho y es capaz de estirarla y además

aceptar el acuerdo con diferentes y no

estamos en un modelo similar al que ustedes han propiciado en navarra porque a mí sí me gusta fijarme en lo que se dice y en lo que se hace eso que usted reclama a los demás de coherencia y les voy a decir una cosa incluso en navarra incluso en navarra

mantienen ustedes el escudo fiscal en el impuesto de patrimonio eso que para ustedes es aquí es un diablo con patas que hay que perseguir y matar ustedes

mantienen el escudo fiscal de protección en el impuesto de patrimonio ya ve cuando les toca decidir no se diferencian ustedes tanto del resto como quieren y esa es la realidad como ustedes hoy siguen temiendo mancharse con ningún acuerdo que no sea

el acuerdo que haga posible que paguen más empresas y que paguen más quienes más ingresan

y las compensaciones y que se potencien aquellas deducciones que estén vinculadas a objetivos que creemos que se tienen que impulsar como es el empleo de calidad

de empleo en este momento en el impuesto de sociedades se vincula no solamente a la contratación indefinida sino también al salario a percibir por el nuevo trabajador

y visto su interés en reproducir estos debates en esta cámara

pues se sumen al partido socialista tiendan la mano y nos la agarre

sea quien fije la estrategia común de los ingresos fiscales de esta comunidad autónoma los socialistas desde luego vamos a seguir trabajando por conseguir y lograr acuerdos hoy por de pronto yo le puedo decir que nos sentimos muy orgullosos los socialistas de poder decirles a la ciudadanía

progresiva y eficaz y a la lucha que se está realizando contra el fraude fiscal disponemos

nuestra educación y mejorar la renta de garantía de ingresos para llegar a aquellos que lo necesitan para acompañar a las empresas que se comprometen con nuestro país y crear

un escenario de sosiego y de certidumbres un poquito de tranquilidad y oportunidades

porque cuando hablamos de fiscalidad señor bollain y señora pinedo lo que hablamos es de esto

que con tanto barniz a veces se olvidan para que vinieron a este parlamento y es para influir y decidir en las políticas de un país porque hablar de fiscalidad es dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos contar con los servicios públicos y prestar los servicios públicos que esos ciudadanos demandan y necesitan hablar de fiscalidad

que nos haga progresar como sociedad justa y cohesionada y desde luego

ninguna duda a ninguno de los dos que en ese camino estamos y en ese camino nos mantendremos muchas gracias eskerrik asko

porque si estaba apelando a los de la izquierda no se ha olvidado de nosotros si estaba apelando a las y los progresistas de este país se ha olvidado usted del pnv el partido más progresista más humanista que puso en marcha

institucional y que ha estado liderando el proyecto institucional de las distintas administraciones públicas vascas y que ustedes podemos de madrid

para presentar en otros ámbitos horrela da eta

galduta ibiliko zara porque no sabe usted la cantidad de gente de izquierdas conservadora hasta las trancas que conozco yo

por tanto ese tipo de articulaciones de los colectivos y de cómo calificamos y clasificamos a la sociedad pues están un poco pasados pero le voy a dar algunos datos porque usted estaba diciendo eta aipatzen dozu

es otra vez políticas para que paguen menos

hau elak ateratakoa la situación en navarra es muy parecida a la comunidad autónoma del país vasco

en euskadi la presión es de un treinta y cinco coma cinco por ciento nafarroan de un treinta y cuatro coma tres por ciento ia berdina y la presión en el impuesto de sociedades euskadin ehuneko hamaikaa

tipo nominala zein jartzen den la baja recaudación del impuesto de sociedades podría tener varias causas las bonificaciones las deducciones la opción de compensar las pérdidas

ejercicios por eso lo importante en el impuesto de sociedades es el tipo efectivo eta hori da egin dena aldaketan hori da egin dena aldaketan

señor damborenea ha dicho que no quería

y ha pasado a otro ámbito nosotros presentamos el partido socialista y el partido nacionalista vasco aquí

en la que pedíamos que este pleno que el pleno monográfico de fiscalidad se celebrara hace ya un año esta semana hará un año de que ustedes bildu y ustedes rechazaron aquel debate nosotros sí queremos situarnos en el debate que en este momento está

nos parece importante que de alguna forma también nosotros podamos avalar eso que además es fruto de un acuerdo de una amplia mayoría política en euskadi no obstante pasa y ha centrado su debate en el ámbito

de españa y creo que usted lo que no

otros datos para poder hacer como le decía la señora pinedo un análisis completo de eso que estaba diciendo

de un sitio y de otro también pero también la voy a dar datos del índice económico de competitividad fiscal que todos nosotros tenemos que es un índice

y solo en relación con el impuesto sobre la renta de las persona físicas en este índice y en relación con la reducciones y deducciones por rendimiento del trabajo bueno primero se parte de la insistencia

lo que dificulta su análisis comparativo al igual que el impuesto de sociedades y no digo ya nada si lo que estamos haciendo es análisis comparativos de sistemas fiscales integrales no obstante vuelvo

las diputaciones vascas aplican una reducción por rentas del trabajo que supera en las comunidades del régimen común

dice la mayor reducción tanto por mínimo personal como familiar se alcanza en las tres diputaciones del país vasco en relación

siguen ofreciendo la mejor reducción para las familias con tres hijos a cargo seguimos tramos y tipo impositivos para las rentas más bajas señor bollain señora pineda tramos impositivos insiste otra vez en lo complicado

porque los tramos dista mucho de ser homogéneos en todos los sitios y dice los resultados revelan que donde menos impuestos pagan las rentas más bajas es en el país vasco seguimos tramos y tipos impositivos para las rentas más altas

el análisis concluye que a excepción de navarra que tiene el tipo más alto de todos le siguen las tres diputaciones del país vasco

donde más tributan es en euskadi y concluye el análisis de los distintos factores en relación con el impuesto de la renta de las personas físicas haciendo una comparativa

del índice del impuesto sobre la renta la ocupan las tres diputaciones del país vasco esa es la realidad en relación con el impuesto de la renta de las personas físicas no obstante como usted bien sabe porque cuando hemos

que ahora están sometidas a debate en las juntas generales de los tres territorios históricos acordamos que ahora lo que convenía y a raíz de la evaluación realizada de los resultados obtenidos de la reforma

y entró en vigor el uno de enero del dos mil catorce convenía hacer de forma inmediata unas actualizaciones fundamentalmente en el impuesto de sociedades y que en un escenario no muy lejano convendría volver a hacer una evaluación de los datos que se den de aquella reforma actualizada con las nuevas modificaciones y valorar si efectivamente es necesario

otra vez algunos impuestos y entre ellos también el impuesto de la renta de las personas físicas todo el sistema

para poder ir mejorando legebiltzarrean eztabaida hau bollain

respetar los pactos y los acuerdos adoptados no entendemos que se adopten acuerdos que luego se incumplen en función de la conveniencia del momento

en el dos mil trece usted ha dicho un acuerdo incumplido y respetaremos este acuerdo

lehendakari legebiltzarkideok egun on guztioi la sesión plenaria que hoy nos reúne supone el cuarto pleno monográfico que sobre fiscalidad celebra este parlamento

de la presente legislatura una legislatura sin embargo en la que en breve espacio temporal se han planteado en esta cámara múltiples iniciativas de impulso y control relacionados con la fiscalidad en la comunidad autónoma de euskadi o con la eventualidad de una reforma fiscal

como bien ha señalado en su escrito de solicitud de pleno los grupos proponentes los debates en torno a la cuestión de la fiscalidad

recurrentes y este pleno monográfico en definitiva viene a ser un corolario de todas esas iniciativas tan recurrentes han sido los debates que no será extraño que mis propias palabras

por ello y en primer lugar quisiera reiterar que este gobierno como no podía ser de otra manera no pone en duda la legitimidad de su planteamiento y también

ni cualquier otro que surja en el parlamento en relación con esta cuestión centraré mi intervención en dos partes diferenciadas primero una breve alusión

de gestación de las modificaciones fiscales consensuadas para los años venideros en euskadi

de las modificaciones fiscales y su encuadramiento guztiok dakizue

ororen finantza nahikotasuna bermatzeko estas mismas orientaciones sustentaron

operada a finales del año dos mil trece y que ha estado vigente durante estos años gracias a dicha reforma tributaria durante estos últimos años se han garantizado los servicios públicos y se ha contribuido a impulsar la economía y a generar empleo y en la presente legislatura el gobierno vasco pretende reafirmar

con la inclusión del compromiso de poner la política fiscal al servicio del crecimiento y la solidaridad y de una iniciativa con estos términos impulsar desde el órgano de coordinación tributaria la actualización

para incentivar la actividad económica la innovación y el empleo y para salvaguardar las políticas públicas y los servicios públicos esenciales

este era nuestro compromiso y lo hemos intentado cumplir desde la consecución del más amplio y posible consenso institucional y político

se ha planteado como consecuencia del acuerdo en materia fiscal alcanzado a finales del pasado mes de noviembre entre el partido nacionalista vasco el partido socialista y el partido popular un acuerdo que se ha trasladado a las juntas generales de los tres territorios históricos a los efectos de aprobar las correspondientes normas forales porque es ahí en dicha instancia donde se deben tomar las decisiones relativas a la fiscalidad como saben

obtuvo un amplio consenso para su formulación y durante estos años se ha aplicado pacíficamente ahora bien tal y como así se planteó cuando se formuló dicha reforma y así se recoge en nuestro acuerdo de gobierno estaba previsto llevar a cabo una evaluación de su resultados

a la actualización de la normativa fiscal y así se ha hecho a este respecto quiero resaltar que tanto el gobierno vasco como las tres diputaciones forales

de dar tres pasos para acometer una eventual reforma fiscal en primer lugar analizar en profundidad los resultados de la reforma aprobada en el año dos mil trece

proponer una reforma que enlace los dos objetivos que todos hemos aprobado es decir mantener los servicios públicos e impulsar el crecimiento económico

esa propuesta en las juntas generales de los territorios históricos con el más amplio consenso posible pero antes de alcanzar un consenso sobre dichas propuestas también tuvimos que compartir un análisis y evaluación

y de las perspectivas de la económica y también las necesidades financieras de las instituciones

eta etorkizunari buruz eta erakundeen finantza beharren inguruan ere todas las instituciones estuvimos de acuerdo en los objetivos a cumplir como en la metodología de trabajo así por tanto en abril del pasado año las diputaciones forales de araba

en sus respectivas juntas generales la evaluación de la reforma tributaria correspondiente al año dos mil trece también anunciaron que estaban trabajando conjuntamente

de medidas tributarias que ajustaría y mejoraría la normativa foral actual

todo este trabajo ha dado sus frutos en cualquier caso debo destacar que las reformas acordadas se han consensuado primero entre las instituciones y posteriormente se han consensuado también entre los partidos políticos

ese esfuerzo de lograr un acuerdo interinstitucional por tanto se ha trasladado con posterioridad a una negociación entre los partidos políticos como no podía ser de otra manera a la vista de la aritmética de las mayorías y minorías que operan en nuestras instituciones y es lo primero que quiero destacar y darle el valor que merece porque alcanzar

y entre partidos muy distintos después ni es una cuestión menor

lortzen porque a mi juicio dudo que se pudiera alcanzar cualquier otro acuerdo en esta cuestión con un nivel de consenso superior al conseguido por la reforma que ahora se está planteando en las juntas generales

por tanto desde la perspectiva institucional y desde una perspectiva política son unos acuerdos que van a dotar

un entorno de certidumbre y confianza que a nadie se nos escapa constituyen factores básicos para el positivo desenvolvimiento de la economía

que en relación con los elementos nucleares estructurales que regulan las figuras impositivas que se van a modificar va a tener igual traslación prácticamente

ello supone un alto grado de armonización porque en definitiva las reformas acordadas nos van a permitir cumplir con los dos objetivos primordiales

el debate sobre esta reforma fiscal por un lado van a propiciar la suficiencia financiera del gobierno y del conjunto de las instituciones de euskadi con el objetivo de mantener y mejorar las políticas públicas y a la calidad de los servicios públicos tales como la salud la educación y la protección social

además también debo recordar que esta actualización de la normativa fiscal se ha llevado a cabo tras la reciente modificación de la ley de concierto económico ratificada en la comisión mixta

con la variación de más de veinte artículos que suponen mejoras en la capacidad de la gestión tributaria de las diputaciones forales y en la coordinación entre las administraciones tributarias

deseo reiterar que a pesar de los datos definitivos de recaudación correspondientes a dos mil diecisiete ratificados ayer mismo por el consejo vasco de finanzas públicas y cuya lectura puede abrir caminos de micro euforia

de adopción totalmente necesaria ya que el fantasma de la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria

aún más nuestro margen de ingresos al menos en los próximos ejercicios al propio tiempo lanzar la inversión pública sin deterioro de los márgenes de competitividad es realmente necesario

debo reiterar igualmente que a mí juicio el pacto fiscal alcanzado es además de necesario sólido realista y positivo ya que aporta estabilidad a la sociedad

creo que es un acuerdo que reportará no solo certidumbre y seguridad jurídica sino también los recursos suficientes que garanticen que podamos seguir prestando

acordada incorpora medidas en relación a los diferentes impuestos sociedades irpf patrimonio sucesiones y donaciones

más aún cuando deben ser debatidas como decía en las juntas generales de los territorios históricos

aunque sí me gustaría llamar la atención sobre ciertos mensajes demagógicos y por tanto falsos que se han vertido en torno a esta reforma fiscal y además en algunos casos

de la misma así algunas voces han advertido que la reforma acordada va a suponer una merma de nuestra recaudación tributaria o que es una reforma auspiciada

se ha focalizado el debate tanto político como mediático en el tipo nominal del impuesto de sociedades

simplistas la fiscalidad también como se ha dicho esta mañana aquí hay que analizarla en su integridad así por ejemplo en el ámbito del irpf seguimos compartiendo el objetivo

en las clases medias y bajas y en relación al impuesto de sociedades no debemos pecar de ni de limitarnos a examinar

cuando la recaudación de este impuesto depende de varios factores el tipo nominal

las deducciones el número de empresas los resultados de las empresas el control de la elusión o el tipo efectivo y si analizamos el impuesto en su conjunto

con más inversión con más empresas y empresas más competitivas con esta reforma del impuesto de sociedades lo que se pretende es garantizar el equilibrio entre un impulso que debe tratar de incentivar la actividad económica y generar empleo de calidad por un lado y garantizar la principal función que corresponda al impuesto que es la de recaudar por otro

como ustedes bien saben es decir con lo que realmente pagan las empresas por sus beneficios el tipo nominal se ve alterado con otras series de medidas contempladas en el impuesto de sociedades que son las que permiten incrementar

disminuir la recaudación fiscal y además esta reforma del impuesto de sociedades introduce otras medidas que siguen las actuales tendencias europeas sobre la fiscalidad

ha aportado una serie de medidas enfocadas a evitar la elusión y la evasión fiscal la erosión de las bases imponibles y el traslado artificioso de los beneficios empresariales siguiendo las recomendaciones de la ocde y de la unión europea y alineándonos

leku aldatze maltzurra eragozteko bideratutakoak así por ejemplo podemos citar la revisión de los artículos relativos a la eliminación

y otras medidas como la limitación de la compensación de las bases imponibles negativas así mismo se limitan la aplicación de deducciones y la exención

únicamente a los activos fijos con finalidad vinculada a la actividad económica de la empresa por otro lado

adaptarse incluso antes de la fecha obligatoria de transposición el año dos mil veinticuatro a la nueva directiva de la unión europea por la que se establecen

interior como les he dicho además de incrementar la recaudación también es esencial incentivar la actividad económica por ello se han acordado medidas

a la calidad del empleo y al salario o la inclusión de la regulación necesaria para la creación de fondos que incentiven la innovación son tan solo algunos ejemplos de la letra pequeña de esta reforma

la reducción de los tipos nominales del veintiocho al veinticuatro por ciento para el tipo general

reducción que además se ha pactado hacer en dos tramos una parte en el año dos mil dieciocho y otra parte en el año dos mil diecinueve y es cierto sí que

pero no había solicitado un incremento del tipo mínimo y también se ha aprobado no había solicitado la eliminación de determinadas deducciones que también se han aprobado

la limitación de bases imponibles negativas ni la limitación de los gastos financieros ni de determinadas deducciones y también se han aprobado dichas medidas además valoremos como lo valoremos también hemos de ser conscientes que la reducción del tipo nominal puede generar unas expectativas positivas en las empresas

e impulsar la actividad y el empleo por otro en definitiva las medidas que se han acordado permitirán en euskadi tener un tipo nominal del impuesto de sociedades atractivo al mismo tiempo que un tipo efectivo superior y en consecuencia incrementar la recaudación del impuesto en cualquier caso la evolución de la recaudación del impuesto sobre sociedades no se debería atribuir únicamente a las medidas fiscales que puedan adoptarse ya que lo principal

que esas empresas tengan beneficios por lo tanto con esa reforma se ha pretendido equilibrar

moderna y acorde con los estándares anti elusión europeos pero sin que por ello perdamos atractivo ni recaudación erreforma honek sozietate zergaren balantza

eta diru bilketa galdu gabe porque hay que decir con claridad que esta reforma no tiene por qué suponer una merma de la recaudación no tiene por qué ser así y estoy convencido de que no va a ser así

y este a su vez a un crecimiento del empleo y de la calidad del empleo la recaudación fiscal no se va a ver afectada negativamente por el contrario la combinación de la positiva evolución prevista en nuestra economía por las modificaciones tributarias pactadas

a las empresas vascas emprender procesos de reversión o acometer dinámicas de adecuación salarial por ejemplo que redundaran también positivamente en la recaudación y así consolidar y optimizar en su caso las políticas y los servicios públicos esenciales que este gobierno firmemente comprometido a salvaguardar en especial en los ámbitos de la salud de la educación o de las políticas de cohesión social desde el punto de vista por tanto resulta

la realización de recortes presupuestarios como se ha comentado porque no es cierto y creo que tampoco es cuestión

la presión fiscal será la que tenga que ser para cumplir con los objetivos que se pretenden

por lo que necesitamos seguridad y incertidumbre jurídica

la certidumbre y la confianza por la responsabilidad que hemos demostrado al preservar la estabilidad y evitar convertir el tema fiscal

e instituciones por la certidumbre que supone haber impulsado la actualización de la normativa fiscal precisa para incentivar la actividad económica

y para salvaguardar las políticas sociales y los servicios públicos esenciales por la confianza como elemento fundamental de estabilidad para el sistema económico

un nuevo acuerdo por la confianza en el escenario de ingresos fiscales aprobado en el consejo vasco de finanzas con el acuerdo unánime de todas las instituciones por la confianza en el escenario que conjuga el equilibrio que permite garantizar los servicios públicos

para crear empleo tanto el gobierno vasco como las diputaciones forales como los partidos políticos que han suscrito este acuerdo en materia fiscal

que cualquier ajuste o mejora de nuestro sistema tributario debe perseguir y compartimos la necesidad de alcanzarlos concitando el mayor grado posible de consenso institucional

y también compartimos que cualquier modificación de la normativa fiscal se haga de manera armonizada para el conjunto del país todo ello con el fin de lograr la necesaria suficiencia financiera interinstitucional

y crear empleo y todas estas medidas que han sido acordadas entre las instituciones y asimismo entre los partidos políticos representan un compendio de medidas

y reales creo que hemos logrado avanzar siempre desde el consenso y el acuerdo hacia el logro de una fiscalidad más moderna y homologable a los países de nuestro entorno

que ustedes hacen guardar dinero para cuando haya vacas flacas pero cómo guardan ustedes dinero multiplicando la deuda por dieciocho en diez años por ejemplo es así la manera que tienen ustedes de guardar dinero no lo sé y luego decían que el pnv respeta los acuerdos ya le digo yo dónde está ese foro para traer a este parlamento el debate sobre fiscalidad acuerdo tomado en el año dos mil trece

se han realizado modificaciones fiscales y de ese foro ni de ese debate en el parlamento

porque lo hemos traído entre elkarrekin podemos y eh bildu el partido nacionalista vasco cero

luego el señor damborenea con el señor damborenea qué le voy a decir yo señor damborenea pues

de entender temas como la justicia social o la redistribución de la riqueza al fin y al cabo tenemos una percepción completamente diferente yo soy una persona de izquierdas usted es una persona liberal pero

para mí por ejemplo la redistribución de la riqueza es un elemento esencial para la justicia y para la cohesión social para usted pues usted prefiere de un modo liberal bajar impuestos pero ahí no se diferencia solo conmigo como le decía no soy yo solo sino el mismo señor

un radical comunista ni mucho menos en este apartado estaba de acuerdo conmigo y

que las administraciones vascas deben poner en marcha todos los instrumentos que tenemos en nuestras manos en materia de fiscalidad para lograr incrementar la recaudación y que teniendo en cuenta que la presión fiscal en euskadi no es mayor que en españa y es menor que en europa

una vía para hacer algo lo que pasa es que ha hecho completamente lo contrario el señor azpiazu porque usted decía que el diferencial no está solo o en su mayoría en el

pero si ponemos los números del impuesto de sociedades sobre la mesa de forma objetiva la presión fiscal en el impuesto de sociedades en euskadi representa

un uno coma siete por ciento en el estado español un dos coma cuatro por ciento del pib y en españa un dos coma seis por ciento del pib es decir en euskadi

puntos porcentuales por debajo que la media de la unión europea respecto a la presión fiscal del impuesto de sociedades y ahí sí hay una vía muy grande para hacer algo como decía el señor azpiazu pero que finalmente pues no ha hecho

que euskadi irlanda rumanía bulgaria lituania y letonia son esos los países a los que queremos parecernos yo creo que no

el impuesto de sociedades aportaba el catorce coma siete por ciento del total de la recaudación de las haciendas vascas en dos mil dieciséis solo un siete coma siete

que la reforma ha sido buena bueno vamos a poner

vamos a poner los números sobre la mesa el consejo vasco de finanzas publicas en octubre de dos mil diecisiete fijó la previsión de recaudación en catorce mil trescientos sesenta y siete millónes de euros han sido ciento seis millónes menos de lo que realmente

millónes de euros pero de los cuales novecientos treinta y siete son coyunturales

de los cuales a su vez seiscientos se deben a la liquidación del cupo

por tanto la recaudación sin efecto cupo ni ese crecimiento

si comparamos este dato con el dato de mayor recaudación hasta el momento que es el de dos mil siete

vemos que la recaudación en el año dos mil diecisiete ha sido doscientos treinta y seis millónes inferior no juguemos no nos hagamos cartas

solitario entonces está usted segura de que la reforma fiscal ha funcionado bien

que vamos bien cuando no se ha recaudado en términos reales ni lo que se recaudó hace diez años otra parte más importante aún los ingresos fiscales en términos reales no se han recuperado

si comparamos los ingresos de las haciendas vascas en dos mil siete

según el propio eustat debiéramos de recaudar este año

de euros y no los catorce mil cuatrocientos setenta y tres millónes de euros es decir

de lo que realmente se debería recaudar no nos hagamos trampas

en las diputaciones conviene señalar que con la información que disponemos los objetivos de suficiencia de recaudación de equidad y de redistribución cada vez están

su planteamiento es que se reduzca del veintiocho al veintiséis y del veintiséis al veinticuatro

menos de lo que se podría y debería ustedes plantean una reducción de recaudación

y otros cuarenta y dos millónes en dos mil veinte en total ochenta y cuatro millónes luego hacemos ese juego trilero y décimos que la modificación de deducciones nos permitirá

que de momento está por ver pero señora castelo también está por ver cómo se comportan esas deducciones a futuro y está por ver si las mediciones tienen suficiente base o no pues tal como no lo digo yo el propio

que no es posible medir los efectos económicos de todas las medidas

y que se trabaja con bases de ejercicios pasados y alguna de estas medidas ni existía claro pero lo que sí sabemos según las estimaciones también aportadas

por impuesto de sociedades sesenta y nueve coma dos millónes de euros en dos años el ochenta y dos por ciento de la pérdida de recaudación será

es decir serán las grandes empresas las beneficiadas de esta rebaja qué sorpresa verdad señor damborenea qué sorpresa va a ser que sus propios informes los del partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi dicen que su reforma fiscal beneficia a los de arriba

mil millónes de euros menos de lo recaudado en dos mil siete y hoy

no llegaremos ni llegamos a esas cifras de hace una década y no llegaremos precisamente

a la patronal y a las grandes empresas la conclusión de que el señor rementeria y confebask

no solo se materializa en que no vayamos a tener más ingresos sino que además

decenas o cientos de millónes de euros que son imprescindibles para perseguir los fines de suficiencia de ingresos de equidad de eficiencia y de redistribución de la riqueza señora castelo me hablaba usted de una enmienda de un año atrás

pero ustedes tiene capacidad para traer un pleno monográfico a este parlamento no el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

salvo que nosotros vengamos a otra cosa y decía me parece que vienen a otra cosa llega usted muy tarde señor bollain voy a leer textualmente el acuerdo de gobierno promoveremos la realización de un pleno monográfico de fiscalidad en el parlamento vasco

modificación fiscal pnv pse a qué espera usted señora castelo

que es cuando llega la reforma fiscal no hace un año o es que solo cumplen cuando manda el pnv acordar con el partido popular decía usted también que podríamos coincidir en las líneas generales espero que hoy ustedes voten a favor de nuestras resoluciones

y así les tendemos nuestra mano una vez más y luego me hablaba de realismo me decía que intentase sumar claro que intento sumar pero si euskal herria bildu elkarrekin podemos y el partido socialista de euskadi sumamos señora castelo ya sabe usted pero no

que hacer es lo que tienen que hacer ustedes es cambiar de aliados no se alíen con la derecha alíense con las fuerzas progresistas y así podremos llevar adelante su programa electoral el nuestro y el de euskal herria bildu pero sabe usted

y hoy voy acabando ya catorce de febrero día de los y las enamoradas

del partido socialista les animamos a que sean abiertas en sus relaciones

no se resignen a una relación de subordinación con la derecha señoras y señores del partido socialista atrévanse déjense llevar por su corazón

y experimenten prueben otro tipo de relaciones más abiertas y sanas más coherentes con sus sentimientos y sobre todo más coherentes con sus principios escojan a las fuerzas progresistas de este parlamento por favor

egun on guztioi berriz ere la verdad es que me ha sorprendido escuchar a algunos de los portavoces decir que los proponentes no veníamos a hacer un debate fiscal pero que ellos sí porque yo no les he escuchado hacer un debate fiscal a ellos tampoco yo por lo menos he puesto propuestas encima de la mesa ellos

lo han hecho suficiente algunos más que otros como siempre siempre los mismos y las mismas de acuerdo vamos a intentar ir por orden señor damborenea

la verdad es que mire usted y yo nos conocemos y sabemos de qué vamos cada uno usted es de derechas y punto y baja usted aquí y defiende postulados de derecha

me parece estupendo pero usted sabe perfectamente que yo soy de izquierdas y por lo tanto defendemos postulados distintos y vuelvo a decir usted me viene en españa ya se ha bajado el irpf usted sabe tan bien como yo por qué verdad

un acto electoral un acto electoral señor damborenea y desde europa les dijeron que a ver de qué iban ustedes

el número se le ha ido mucho creo que ha cogido la referencia del estado pero bueno es normal viniendo del partido popular que coja la referencia del estado

y otra vez vuelve a decirme lo de siempre y es lo que ya les ha puesto ustedes al pnv y al pse encima de la mesa respecto al irpf nosotros queremos que el dinero

claro que ya de hablar de subir los sueldos ya de eso mejor ni hablar

eso ya es harina de otro costal como dice un amigo mío señor damborenea me pone de ejemplo a madrid donde no hay impuesto de patrimonio no hay impuesto de sucesiones

bahamas o alguna de estas porque al final es usted a lo que me quiere llevar me dice es que con sus propuestas se van

y usted estará encantado de la vida y los ricos no le quiero ni contar

ese el problema es que tenemos modelos de sociedades distintos cuando usted dice que hay que devolverle a los ciudadanos lo que han perdido

de su estado español porque ustedes hicieron

a aquellos amigos que ustedes tenían en diferentes cajas de ahorro dentro del estado español y ahí tenemos un montón de causas abiertas caja del mediterráneo caja castilla la mancha caja de ahorros de madrid

señora castelo yo entiendo su postura usted tiene que venir aquí que ustedes hacen lo que el partido socialista siempre tiene que hacer los socialistas estamos contentos porque somos la única izquierda que garantiza una fiscalidad justa y estabilidad

tela tela lo que ha venido usted a decir aquí cuando ustedes dijeron que era su línea roja no bajar el impuesto de sociedades y en una semana lo habían cambiado ustedes

y en cuanto les ofrecieron sillones calentitos ustedes fueron

ustedes me vienen a mí a decir que son la izquierda que garantiza fiscalidad justa

a disculparnos por no haber acordado presupuestos no señora castelo de eso nada y ya se lo dije en el debate

que volvamos a entrar en ello usted sabrá por qué lo ha firmado cuántos asientos

ni nunca señora castelo la reforma fiscal es buena y funciona es tan buena y funciona que hasta el último año

ni uno ha cumplido sus propias precisiones de recaudación es más en el dos mil quince y dos mil dieciséis en suma

y este año se ponen ustedes la medalla porque han conseguido cumplir los objetivos evidentemente lo he dicho en mi primera intervención porque se pusieron objetivos más razonables

porque sabían lo que venía y claro cuando la economía crece no tiene ninguna novedad

recaudar más porque la propia economía te lo da no porque tú pongas

crezca no hablan del tipo nominal porque ese no es su debate

desde junio hasta octubre debatiendo sobre el tipo nominal del impuesto de sociedades

y aquí tan amigos eso es lo que están haciendo ustedes señora castelo lo de la interconexión entre diputaciones venga sí no había ninguna propuesta verdad en el órgano de coordinación tributaria previo de una diputación gobernada por eh bildu la había pero ustedes y el pnv se habían encargado

porque ustedes una vez más como siempre se querían poner la medalla y otra vez con la recaudación miren ha subido en los últimos diez años más de tres mil millónes de euros

y la recaudación ha subido apenas cien millónes de euros

que su contrarreforma fiscal ha traído suficiente presupuestaria mayores ingresos de recaudación de verdad

y solo han conseguido recaudar cien millónes más hombre por favor

señora gorospe usted se olvida que el impuesto de sociedades lo cambió un diputado general del pnv

por decreto en contra de la opinión de las juntas generales de gipuzkoa y en contra de la opinión del diputado de hacienda que sí era en aquel momento miembro de eusko alkartasuna y usted olvida que ustedes

que durante dos años estuvo en gipuzkoa a diferencia del resto de territorios porque ea mantuvo el impuesto de patrimonio y lo quitaron

por decreto por lo tanto no me venga usted a mí

yo también sé historia y hoy han cometido las dos el mismo error queremos converger en los tipos de europa

de la presión fiscal europea pero claro a ustedes les gusta mucho más hablar del tipo de sociedades y demás que encima nos hacen trampas

que lo de la derecha y los progresistas es como el mejor truco del diablo

fue convencer al mundo de que no existía pero todos sabemos que está ahí y eso es lo que pasa con la derecha y ustedes

por lo menos aquellos señores lo dicen pero usted me baja aquí y me habla de progresismo hombre por favor hombre por favor ustedes pactan con la derecha y están encantados con la derecha

ustedes son los que hacen todo ese tipo de políticas económicas de derechas porque ustedes lo quieren por voluntad propia

ez dizue inor horretara behartzen zuek egiten duzue pero luego resulta que vienen a euskadi

el diputado general de álava llorando porque es que el superávit fíjese usted por la ley de la regla de gasto la tenemos que desviar a deuda pero si lo han hecho ustedes

y es que siempre nos vienen con la misma siempre nos vienen con la misma

popular en contra del monográfico que lo han hecho exactamente las dos está claro que está muy bien coordinado el gobierno porque

zerga politikaren inguruan debate publikoa irekitzeaz me temo que no me temo que no porque ustedes una vez más quieren hacer lo de siempre lo que vienen haciendo siempre

en relación al tema del viaje del diputado general de bizkaia a madrid va mañana sí va mañana

de verdad me quieren hacer creer que les va a decir señores hemos aprobado una reforma fiscal para que ustedes

que me quieren hacer creer eso pero ustedes qué se creen que nos hemos caído de un guindo

hace mucho tiempo porque les está haciendo los deberes a la derecha usted está haciendo los deberes a la derecha mire ustedes van que han conseguido una reforma fiscal mejor más competitiva cuando en realidad si le pusieran el traductor simultáneo que se utilizaba se acuerdan ustedes en vaya semanita aquel traductor simultáneo diría señores bizkaia gipuzkoa grabazio akatsa fiscales que ustedes querían

y pretenden que la sociedad se crea que van a pagar más impuestos pero que van a hacer un acto público en madrid

evidentemente lo de cataluña ya se encargará el partido popular que si no le gusta lo que sale aquí ya grabazio akatsa un nuevo decreto para que las empresas se vayan de euskadi como se han ido de cataluña por decretos del partido popular

engañar a la sociedad con medidas que ustedes saben a ciencia cierta que solo solo solo benefician a sus amigos

el concierto económico y quitarles las competencias que sí son derechos históricos de los territorios forales para pasárselos a este parlamento es evidente que ahí no vamos a coincidir con ustedes nunca pero ni aquí ni en otros sitios

la finalidad de la política fiscal es garantizar los servicios públicos que es lo que usted nos ha dicho pero claro eso es la recaudación

y sí nos diferenciamos en algo porque nosotros décimos que lo primero que hay que hacer es primero saber de cuánto dispongo y luego entonces tanto gasto

cuánto me voy a gastar necesito esto cómo lo saco pues ya veremos subimos y eso es una mala política fiscal porque

cuando fiscalmente se fomenta que la actividad económica crezca no cuando se asfixia y por eso también ahí nos distinguimos de ustedes nosotros sí creemos

que la fiscalidad debe favorecer el empleo y debe favorecer el crecimiento de las rentas familiares disponibles que la gente iba mejor pero la fiscalidad y todo

hay otros que piensan más en la administración y el gasto de la administración pero bueno segundo

voy a repetir el debate que tuvimos en diciembre sobre el pacto fiscal que habíamos alcanzado porque ya lo tuvimos con estos señores en diciembre y no lo hemos tenido en enero pues porque no ha habido plenos lo tenemos en febrero y supongo que seguiremos

con la misma matraca del tema ahora yo sí voy a decir una cosa claro que va haber empresas que van pagar menos impuesto de sociedades

lo cual no significa que no se recaude más que también me apuesto con el señor bollain si quiere dentro de año y medio

cuando menos perplejo de reformas y contrarreformas el pacto fiscal que hemos alcanzado entrará en vigor el uno de enero de este año afectará a las empresas en sus declaraciones en el año que viene en el dos mil diecinueve

es que también habría que ver de qué estamos hablando o de qué se quiere hablar cuando se habla de mayores o menores recaudaciones todo el mundo sabe que una reforma fiscal hasta prácticamente dos años no tiene efectos reales

sí es un anuncio de lo que va a pasar y sí da estabilidad a las empresas para saber en qué marco jurídico

y por eso en fin pero yo pongo en valor ese acuerdo cómo no lo voy a poner en valor si la propuesta inicial que plantearon los socios de gobierno era dejar el impuesto como estaba quitar deducciones y empeorar las situaciones de las empresas porque

de por qué se van las empresas de por qué se van los contribuyentes sí

datos de la diputación foral de gipuzkoa contribuyentes en el año dos mil catorce

menos seiscientos cuarenta y cinco grandes fortunas

y ahora pagan impuestos en otro sitio y esto no ha sido un decreto del pp esto ha sido la política fiscal de bildu en gipuzkoa avalada eso sí por el partido socialista que es el acuerdo al que habían llegado

señora gorospe yo el estudio ese que me ha sacado es el mismo que nos sacaron por cierto aquellos señores para decir que no había que tocar los tipos del impuesto de sociedades yo no sé quién lo ha hecho

el tipo mínimo está en el diecinueve por ciento el diecinueve porque usted me dice que según ese informe tenemos los tipos más bajos

en el veintitrés diecinueve por ciento

oiga tres puntos más en las rentas más bajas en el primer tramo y a partir de aquí

en madrid está en el diecinueve la más baja y aquí empezamos en el veinte

entonces no sé qué estudios ahora eso sí

van dando la sensación por ahí de que esto es un paraíso fiscal el paraíso foral fiscal debe ser que en su momento sí que lo fue hasta que llegaron los nacionalistas a gobernar y gobiernan porque claro antes sí se pagaban menos impuestos aquí

no hace tantos años que el impuesto de sucesiones estaba en cero para que esas grandes fortunas que algunos dicen vinieran de españa a aquí ahora está al revés está a cero en madrid y aquí lo tenemos gravado con lo cual si además les ponemos

pues hacemos una fenómena recaudación cero cero

o las dos cosas y hay mucho cenizo por aquí pero le repito yo le apuesto a usted dentro de año y medio

una comida una cena lo que usted quiera a que vamos a recaudar más en el impuesto de sociedades

yo le hago la apuesta luego usted haga lo que quiera y señora pinedo tenemos modelos distintos pues por supuesto el suyo es empobrecer a la gente claro

se lo quito sí sí empobrecer a la gente dice no es que aquí somos robin hood ustedes van de robin hood empobrecer a la gente mire el nuestro no es empobrecer a nadie el nuestro es que a todo el mundo le vaya mejor

y rebajando el tipo por ejemplo como madrid tres puntos a los que menos ganan claro a los que no llegan a veinte mil euros claro esa es nuestra propuesta

queremos que la gente pague lo justo para mantener unos servicios esenciales básicos y necesarios

ni que nos gastemos mucho dinero en cosas que no nos sirven para nada y en este presupuesto de este gobierno hay muchos y claros ejemplos sí sí empezando por la televisión pública

no estamos haciendo debate fiscal hombre nosotros sí nosotros le estamos planteando que queremos bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas adecuarlo

del resto de españa no les voy a decir madrid paraíso fiscal ahora donde los haya claro es que madrid ahora resulta que es un paraíso fiscal hay que jorobarse oiga

equiparamos algo y crecemos como crece madrid en número de empresas y en empleos cosa que aquí no hacemos

preguntará por qué las empresas prefieren irse a madrid y no venir aquí verdad

se les escapan perdón echan a seiscientos cincuenta altos contribuyentes de gipuzkoa y no le preocupa lo que quiere es que lo traslademos a bizkaia y álava a ver si nos pasa lo mismo eso es su planteamiento

pero que paguen aquí sí y con eso rebajar los impuestos que pagamos todos los demás y el impuesto de patrimonio se lo he dicho en europa si nos lo ponen de referencia que el señor depardieu

para no pagar patrimonio en francia será que en rusia tampoco hay

por qué será nosotros queremos que todo el mundo pague que pague lo suyo pero entendemos que

y ahora que la recaudación va bien las perspectivas económicas van bien si

y es el momento de empezar a valorar que hay que devolverle a la gente es esfuerzo fiscal
que ha realizado y eso se hace bajando el irpf eskerrik asko damborenea jauna

señor damborenea al señor bollain no le gustan los riesgos

que el impuesto sobre sociedades no iba a bajar su recaudación y no se atrevió a aceptarme la apuesta y ahora ya hacía así con la cabeza

no me gusta y no le gusta porque sabe por mucho que maneje datos que están haciendo un discurso demagogo con respecto a lo que va a ser la recaudación

aquí se dicen cosas y sale todo alterado a la tribuna y a decir auténticas barbaridades porque yo creo que mi primer turno no he faltado al respeto a nadie yo lo que he hecho ha sido exponer y lógicamente lógicamente buscar

y que sí se me da bien la historia pero lo que tengo es una facilidad de lectura impresionante y una buena memoria y por tanto

habla o se me pide coherencia en las posturas o en el tema este pues suelo buscar datos de saber si otros

incoherente entonces a mí me hace gracia que alguien salga aquí y me venga a decir que

en navarra porque tienen casi el mismo impuesto de sociedades que nosotros

igual ustedes ahí han llegado a ese acuerdo que nos queda como paraíso fiscal que usted me preguntaba qué nos queda como paraíso fiscal pues nos queda navarra

en un quince por ciento y usted ahí está en gobierno y no parece que eso le importe pero bueno

que a veces los refranes son buenos para darle contestación luego el señor bollain me dice que incumplimos el tema del foro y del monográfico

en febrero del año pasado porque eso descafeinaba la propuesta original presentada por ustedes en aquel entonces

toda la vida porque ustedes dijeron que aquello no era un debate serio ni un formato

etcétera nosotros cuando ustedes vinieron con aquella propuesta de ponencia

les presentamos la oportunidad desde la iniciativa del partido nacionalista vasco y del partido socialista les presentamos la oportunidad de hacer un pleno monográfico pero no les interesaba

no nos dan el mismo discurso es que la realidad es la realidad y la va la señora gorospe y la veo yo

y eso lo venimos detectando aquí desde hace ya

tiempo por tanto no me hable usted de incumplimientos con el pleno monográfico usted no quiso debatir en esta tribuna en febrero del dos mil diecisiete y luego se buscó

una pregunta y hasta que no se han visto forzados al siguiente debate presupuestario no ha llegado aquí un pleno monográfico que ya lo siento si yo no me lo estoy inventando solo hago una recopilación de la historia que hemos tenido reciente

en el último año y ustedes pueden insistir y el señor consejero de hacienda ha intentado dar los datos con respecto al contenido

introducido medidas de elusión fiscal de erosión para impedir la erosión de bases imponibles que no se ha solicitado por nadie que se suba

que se han limitado a las deducciones las compensaciones y que va a aumentar la recaudación y no porque lo diga usted y no porque lo diga usted porque lo dicen los informes técnicos y económicos que acompañan

normas forales que les puede gustar o no gustar y yo no hice primero de matemáticas pero ya he dicho que soy

hoy en día no sé si me sirven más o menos pero como tampoco creo que a la ciudadanía haya que marearla con datos

por informes de técnicos no lo presentado ante la prensa

lo que se viene a decir es que la recaudación total en dos años en el impuesto de sociedades según la previsión que tiene se incrementará en ciento veinticuatro

y del diecinueve para ponérselas a ustedes en la frente y ustedes entonces nos dirán como nos ha dicho hoy la señora pinedo no la reforma del trece no ha afectado a la recaudación no no si no hubiesemos hecho la reforma del trece me quiere decir la señora pinedo que la recaudación hubiera sido la misma

sería capaz de afirmarme usted que ha hecho primero de matemáticas y que además sabe historia

me quiere decir usted que no hubo ninguna medida para mejorar la recaudación hombre

yo que he estado durante la vigencia de esa reforma en juntas generales y hemos tenido

con alguien que seguramente yo no sé si había hecho economía pero sí entendía de impuestos

la posibilidad de mantener los recursos públicos y de tener las prestaciones públicas que los ciudadanos necesitan y en eso si es cierto señor damborenea nos diferenciamos

son menos impuestos y devolver y a nosotros lo que nos interesa es a través de la fiscalidad conseguir la redistribución no sé si usted entiende lo qué es eso pero la redistribución significa que aquellas necesidades que tengan los ciudadanos se cumplan y se cubran desde nuestro punto de vista administraciones públicas nos gusta esa gestión pública no lo vemos como gasto lo vemos como inversión y lo he dicho aquí muchas veces las ayudas a la familia

la sanidad sin copagos la educación accesible a todos y con becas la protección social para todos los que lo necesitan eso es para nosotros la política fiscal

los servicios públicos suficientes y los derechos de la ciudadanía usted está en otro modelo

también es cierto ha sido usted capaz que no han sido otros

de izquierdosos de llegar a un acuerdo cediendo usted posiciones y

sin traspasar señor bollain ninguna línea roja absolutamente ninguna y se lo he dejado claro

ha terminado su alegato y yo voy a terminar el mío porque no necesito tampoco más tiempo para

oye y me ha dado una sensación aquí a toda la bancada socialista de estar en este momento en auge y en alza porque me ha dado la sensación que usted nos pretendía

muchísimo mejor para este momento y es que hechos son amores y no buenas intenciones

tiéndala de forma sincera e intente desde su posición de izquierdas influir junto con nosotros

en las políticas públicas que se ejerzan en la comunidad autónoma vasca ha perdido

no hay dos sin tres o a la tercera va la vencida vamos a ver cuál es el que le tenemos que aplicar a usted en los presupuestos del dos mil diecinueve muchas gracias

damborenea jauna en el acuerdo el pacto el acuerdo que nosotros hemos adoptado

de las medidas las actualizaciones que en este momento están en debate en las juntas generales también acordamos

de dos mil veinte dentro de unos años se analizará el sistema tributario los distintos impuestos

los distintos tributos haya una reforma entre los cuales está el irpf insisto lo que acordamos es que no ahora no

sino en el horizonte de unos años abordemos ese debate como consecuencia de unos datos y usted en relación con el tipo ha hecho lo mismo que ellos hacen con el tipo del impuesto de sociedades

dos impuestos tan complejos que necesitan y requieren un análisis integral de todo lo que es eso por eso en todo momento

del impuesto vacas gordas y vacas flacas bollain zuk aipatzen izan duzu cómo es posible que usted apele a las vacas gordas y a las vacas flacas

durante estos años tanto cuando el gobierno pero claro precisamente por esta política porque durante las vacas gordas y cuando hubo posibilidad el gobierno vasco cuidó y controló muy bien sus cuentas

mínimo y cuando han venido mal dadas ha tenido capacidad para endeudamiento

por su actitud de control en la época de vacas gordas hemos podido resistir

y ahora en aquellos años y ejercicios que los resultados sean buenos tenemos que volver uno

para poder afrontar gastos inversiones que puedan surgir en ejercicios posteriores precisamente por la lógica de

nosotros sí hablamos de subir sueldos bai

no solo es y es muy importante ayudar a promocionar y a potenciar

para que realmente las empresas estén en condiciones de poder mejorar las condiciones

y salariales de las personas que están trabajando y todas las medidas que se vayan adoptando tienen que ir en ese sentido en el sentido de contribuir positivamente a favorecer eso y a que ningún momento sea un impedimento

para que entre las empresas entre las personas que trabajan en esas empresas entre quienes estamos en las instituciones en las distintas administraciones públicas entre todos y todas podamos contribuir en positivo para que euskadi avance